gracias señora presidenta también brevemente para hacer un recuerdo emocionado de iñaki azkuna tuve la suerte de

ocho años él era consejero de sanidad yo era miembro de la comisión de sanidad ya por aquel entonces del parlamento vasco y fueron

capacidad de actuación y además aprobamos interesantes documentos como el plan osasuna zainduz que ha servido para la modernización de la sanidad vasca y donde este grupo parlamentario y sobre todo este parlamentario que tuvo la oportunidad de negociar con el señor azkuna pues yo creo que

un emocionado recuerdo y las condolencias a la familia del señor azkuna señora presidenta

el panorama en cuanto al desarrollo del procedimiento de mediación hay que verlo con optimismo

institucional de la administración de justicia pero queda mucho camino que recorrer en la implantación efectiva de estos procedimientos

yo creo que estamos en un buen momento para trabajar decididamente por este instrumento de presente pero sobre todo de futuro que resuelva problemas personales pero también problemas institucionales o de organización institucional

como es el procedimiento de mediación en este sentido ya se aprobó una directiva del parlamento europeo

en asuntos civiles y mercantiles la importancia de aquella directiva

el acceso a modalidades alternativas de solución de conflictos y fomentar la resolución amistosa de litigios promoviendo el uso de la mediación asegurando una relación equilibrada entre la mediación y el proceso judicial también con fecha de cinco de marzo de dos mil doce el gobierno de españa aprobó el real decreto ley

y a través de esta norma no solo se cumple con la obligación de transposición al ordenamiento jurídico español de aquella directiva

si no que por primera vez en nuestro país se establece un régimen general en materia de mediación para la resolución de conflictos privados hablamos

en un contexto de defensa de una cultura de tolerancia de una cultura de diálogo de una cultura de acercamiento de consensos y también hablamos conscientes de la utilidad de la figura de la mediación para gestionar conflictos interpersonales hablamos de un procedimiento destinado a inculcar a la ciudadanía el valor del diálogo la mejora de las relaciones personales e institucionales sin olvidar el grado de satisfacción que además

cuando resuelven un conflicto sin necesidad de llegar a un juicio a pesar de estar hablando de un procedimiento que supone un ahorro de tiempo de gastos muy considerables respecto a los procesos judiciales a día de hoy prevalece entre la población

sin olvidar cierta reacción contraria de algunos sectores de la abogacía ante el temor de pérdida de mercado en la gestión de conflictos aunque también abogados pueden encontrar su papel desde luego en el asesoramiento en estas fórmulas y además algunos efectivamente así lo han puesto de manifiesto y lo hemos visto recientemente pues algún penalista importante pues que ha hablado de estas cuestiones y que lógicamente con toda la razón supone

también en el país vasco la calidad de la justicia pasa forzosamente por la potenciación de métodos alternativos que se encarguen de aquella

impropia es decir aquella que nunca tuvo que llegar a los tribunales o que por sus características

diferentes al método de la tradicional tramitación judicial es necesario aumentar la conciencia social de la utilización de la mediación

y vendrá además acompañada de una mayor satisfacción en la resolución de muchos conflictos hemos visto cómo comunidades autónomas por ejemplo cataluña o cantabria han sido también pioneras han sido pioneras a la apuesta firme por este procedimiento

legislación desarrollada además de la mediación familiar como la ley de mediación en el ámbito del derecho privado dirigido a extender

entre las personas sin olvidar las campañas de difusión puestas en marcha en determinados lugares el impulso de proyectos pilotos con soporte institucional

de conflictividad bien el elemento imprescindible para que avance la mediación es colocarla al alcance de la población a través de su difusión y ahí es donde pues entendemos que

pues debe de hacer un esfuerzo entendemos que normal y exigible y entendemos también que de alguna pues ya ha proyectado de información

probablemente indirecta pues a través del cauce normal de las páginas web de los medios de comunicación de la radio bueno de la prensa pero también directa esa implantación de una red servicios de información sobre la mediación gestionados institucionalmente podemos hablar de ayuntamientos fundaciones o entidades

etcétera es decir difusión colaboración con los servicios sociales municipales juzgados de paz ararteko policía local ertzaintza lo importante de todas maneras es que la gente conozca la existencia de la mediación y se involucre en

de conflictos entre las personas el hecho de que los ciudadanos se acerquen

existan más procesos además que concluyan favorablemente

tiene que trabajar es necesario una difusión de la mediación entre la ciudadanía vasca que enfatice tanto los

por eso será necesario el diseño de estrategia de comunicación generalista se debe seguir desarrollando la tarea también iniciada

se ha avanzado ya conocemos la situación actual

ofrecido respuestas a unas preguntas en relación con el planteamiento que el gobierno tiene además

trimestre por lo que he podido leer en alguna respuesta parlamentaria de este año dos mil catorce efectivamente en esas claves también entender que leíamos

en una cita importante en relación con las cuestiones de mediación en el país vasco

una apuesta decidida del gobierno vasco para la consolidación de los instrumentos y servicios de mediación existentes queremos

pleno de control a través de esta interpelación en esta fórmula parlamentaria conocer un poco detalladamente cuál es

con qué criterios piensa acometer el gobierno vasco la implantación paulatina de estos instrumentos alternativos de resolución de conflictos como es el procedimiento de mediación entendemos que es una cuestión constructiva que seguramente

parlamentario que es lo que trataremos de buscar desde mi grupo parlamentario en relación con ese impulso y con esa posibilidad de que a través de los instrumentos del gobierno fundamentalmente también en este parlamento dar visibilidad a la mediación e impulsar ese procedimiento que lo que acerca es a las personas y a

de esa cultura de tolerancia esa cultura de diálogo esa cultura de acuerdo muchas gracias señora presidenta eskerrik asko

yo coincido con usted en todo lo que dice cuando entra a ponderar las virtudes las bondades

alternativo al estrictamente judicial para la resolución de los conflictos intersubjetivos usted sabe que la propia

últimamente porque hay procedimientos de mediación que se desarrollan en el seno de los procesos

pero de manera convencional creo que es positivo que podamos hablar de la mediación como un sistema alternativo resolución de conflictos entendiendo que estamos hablando de un mecanismo que no se desarrolla íntegramente

sino al margen del mismo y a través y esto es lo importante de un mecanismo de autocomposición estoy absolutamente convencido de que la satisfacción

consagrado en el artículo veinticuatro de la constitución en buena parte pasa por la promoción de este tipo de mecanismos alternativos como el de la

que hacen posible que los ciudadanos que están enfrentados por un conflicto por sí mismos a través de la colaboración profesional de un mediador puedan alcanzar una solución autocompositiva resuelven por sí mismos los conflictos que le separan sin tener que esperar una intervención de un tercero que puede ser un juez o un árbitro a través de una sentencia o

por lo que se refiere específicamente además al ámbito del derecho penal la fórmula de la mediación resulta útil para extender la idea de las soluciones

en contraposición a la idea tradicional de la justicia retributiva en el ámbito del derecho penal la justicia restaurativa permite aproximar al delincuente a la víctima considera que la víctima tiene efectivamente algo que decir en relación con el delito cometido

del conflicto satisfactoria para ambas partes sin necesariamente tener que arrancar de la concepción vertical que resulta

que considera que la víctima tiene poco que decir en la comisión de un delito o en la

con la comisión de un delito es una vulneración de un derecho objetivo fijado por el estado y que el estado tiene por tanto una capacidad pública para

respuesta retributiva por parte del

precisión que yo quisiera hacer en relación con este asunto cuando se habla de las bondades de la mediación

poner énfasis fundamentalmente en el efecto que supone la difusión de la mediación desde el punto de vista de descargar de trabajo

y es cierto que este es un efecto colateral positivo

la sobrecarga que puedan estar padeciendo los jueces y tribunales el poder judicial se va atenuando se va atemperando y se alivia a jueces y magistrados

redundar en un peor funcionamiento del conjunto del sistema judicial por tanto este es un efecto innegable que produce hay quien además de aquí extrae otra conclusión

la sobrecarga de trabajo de los jueces y tribunales disminuye los costos que el sistema judicial reportan para el sistema público se reducen también pero estos son efectos que efectivamente se producen pero yo creo que no son ni de lejos los más importantes

la mediación es sobre todo no tanto en lo que puede suponer de descarga de trabajo de los tribunales que insisto es un efecto positivo plausible innegable

como en la medida en que proporciona a los demandantes de justicia una solución alternativa que puede acomodarse mejor a sus necesidades y aspiraciones

al justiciable la posibilidad de elegir de optar entre el proceso en sentido estricto o una fórmula alternativa autocompositiva de la que pueden resultar beneficios para todas las partes implicadas porque a través de la autocomposición las partes litigantes las partes enfrentadas las partes en conflicto

actores principales en la búsqueda de la solución que finalmente consiguen y esto tiene un efecto doble positivo por una parte garantiza

en la medida en que quien participa activamente en la construcción de la solución

con esa solución que cuando esta ha sido adoptada a través de un laudo o de una sentencia judicial y por tanto la garantía de que se cumplirá lo acordado

es mayor pero por otro lado en algunos ámbitos conflictivos intersubjetivos aporta además una cualidad muy importante y es que

a las partes litigantes atenuando de alguna manera los rigores emotivos que puedan resultar del enfrentamiento judicial el enfrentamiento judicial sobre todo por ejemplo

o entre actores económicos que están llamados a mantener una relación comercial

que supone el recurso a la mediación y el uso de la fórmula autocompositiva

más importante deberíamos destacar de la mediación es sobre todo lo que supone de fórmula alternativa que permite al ciudadano en conflicto elegir

una fórmula autocompositiva con garantías de eficacia y además con mayores satisfacciones desde el punto de vista personal me ha parecido entender

que consideraba que la legislación dictada en el estado en el ámbito de la mediación civil y mercantil viene a constituir algo así como el principio de una nueva era

pero afortunadamente en euskadi la mediación la criatura de la mediación

hay muchas iniciativas públicas de mediación impulsadas desde el gobierno vasco en muchos ámbitos con servicios de mediación que están teniendo resultados

positivos siempre altamente valorados por los ciudadanos el servicio de mediación familiar por ejemplo

es un servicio con unos resultados excelentes desde todo punto de vista

es un servicio gratuito universal voluntario atendido por un cuadro de profesionales de diferentes formaciones académicas y experiencias profesionales que está siendo altamente valorado por la sociedad está el servicio de mediación penal

los servicios de mediación intrajudicial están los servicios de mediación hipotecaria que puso en marcha el gobierno anterior y que este gobierno está manteniéndolos

los servicios de mediación públicos proporcionados por el gobierno

son numerosos y están funcionando bien y arrojando excelentes resultados y cuentan con toda la difusión y con toda la promoción que tiene el respaldo institucional que reciben aparte de eso lógicamente este gobierno y en el marco de la legislación dictada por el estado por las cortes generales y usted ha citado el real decreto ley cinco barra dos mil doce y la propia ley

cinco barra dos mil doce de seis de julio en el marco de esta nueva legislación este gobierno conjuntamente con el grupo europeo de magistrados por la mediación ha puesto en marcha una iniciativa en los seis partidos judiciales de gipuzkoa para impulsar la mediación intrajudicial y también conjuntamente con los colegios de abogados y la asociación del derecho colaborativo de euskadi ha puesto en marcha unos cursos de formación

para que desarrollen habilidades y adquieran conocimientos en el ámbito del derecho colaborativo que es uno de los espacios en el que se mueve la mediación por tanto el gobierno se está moviendo está impulsando más allá incluso de lo que supone la existencia desde hace ya mucho tiempo de servicios públicos de mediación que están arrojando un excelente resultado está trabajando en la línea de fomentar de difundir de

la existencia de estas fórmulas alternativas de resolución de conflictos que insisto además del efecto positivo

también proporcionan una satisfacción personal a los litigantes a las partes en litigio que no se puede negar y que está en el núcleo de la alta valoración que debemos depararle

señora presidenta sí gracias señor erkoreka por sus notas por sus apuntes por su valoración desde luego en relación con esta cuestión y por el planteamiento que el gobierno tiene

del principio de una nueva era no he hablado de una directiva europea y de su transposición por la legislación del estado y en ese sentido enmarcar y contextualizar esa labor que se ha ido desarrollando pero que en dos mil ocho europa

como clave y que todos los demás a partir de entonces comunidades autónomas o estados pues supongo que seguirán esa línea decía hace poco o leía yo es realmente ventajoso este sistema de la mediación bueno pues un profesor un penalista un importante un criminólogo un experto

incluso en el ámbito penal destacaba este

apenas unos pocos delitos como la violencia de género no podránsometerse a esta cuestión lo decía

es importante es una vía importante que hay que potenciar y además un coste para los ciudadanos hablaba él también en el marco de lo teórico hasta diez veces inferior que

efectivamente además es beneficioso en ese sentido ya material no solamente en el personal y en el esencial pero sino también incluso

hemos hecho esta interpelación constructiva absolutamente y de estimular una posición activa del gobierno

nuestra actuación para la que estamos preparados como usted ha dicho nosotros

independientemente de que se está actuando es darles visibilidad darles importancia relevancia desde el ámbito también parlamentario y queremos acordar

esa visibilización ese enfoque constructivo de un instrumento que va a servir además

y de la solución de los conflictos entre las personas además entendemos que eso está aceptado asumido y además querido e impulsado por la judicatura fiscalía por la propia doctrina por los propios teóricos del derecho que ya se han pronunciado

a la vista de esa cultura del diálogo queremos impulsar esa visibilización yo creo que ya hemos visto también las informaciones de la página web del consejo general del poder judicial

o lo completo que estamos en las tres provincias en relación con los determinados tipos de mediación la mercantil la social la civil la penal es decir hay cosas todavía por las que avanzar y eso esperamos que haga el gobierno el gobierno efectivamente ha hablado que el segundo trimestre de dos mil catorce iba a ser

un mes un trimestre un tiempo importante y sí que nos gustaría incidir un poco en esa cuestión en relación con lo que va a hacer el gobierno en segundo trimestre de dos mil catorce efectivamente hablaba en una respuesta

se refería la mediación social a la mediación mercantil por dónde va a avanzar cuáles son esas líneas y desde luego también desde el gobierno se estimule ese acuerdo que en una moción que trataremos de propiciar en las próximas semanas cuando la mesa tenga a bien colocar la moción que presentaremos

eskerrik asko legebiltzarburu anderea efectivamente señor barrio le reconozco

a pesar de que estamos en una comunidad autónoma que tiene una larga trayectoria y puede exhibirla además con orgullo de puesta en práctica de experiencias públicas de mediación nos parece que la apertura efectivamente que supone la aprobación de una normativa de estado que dota

es oportuno efectivamente abordar esta cuestión y prestarle la atención que merece ciertamente en mi intervención anterior he querido distinguir lo que es la mediación como servicio público de la mediación como posibilidad privada alternativa de resolución de conflictos lo que

nueva normativa del estado a impulsos de la directiva comunitaria a la que usted ha hecho referencia es la difusión bueno la regulación de los servicios perdón la regulación de la mediación civil y mercantil

pero en el ámbito privado esto ha planteado un cierto conflicto a la hora de determinar exactamente qué espacio normativo ocupa qué títulos competenciales invoca el estado para llevar a cabo esa normativa y cuáles en contra deja en manos de las comunidades autónomas para poder abordar esa misma regulación para la mediación civil y mercantil en los ámbitos en los que puedan ser competencias

pero bueno para abordar esta cuestión yo creo que tiene la cámara una ocasión excelente ahora que se ha creado una ponencia para abordar el derecho civil vasco en el seno de esa ponencia podría entre otras cosas estudiarse la posibilidad de desarrollar mecanismos de mediación específicos

para el ámbito del derecho civil vasco en la medida en que la aplicación

pueda general conflictos intersubjetivos que requieran una solución

con arreglo a los mecanismos judiciales o alternativamente a través de los mecanismos de mediación

parlamento pueda contribuir al diseño general del marco normativo sobre la mediación civil y mercantil pues existe esa posibilidad que está abierta y tendría que

de esa ley de derecho civil por lo que se refiere a los servicios

públicos de mediación le puedo asegurar que el gobierno está trabajando seriamente a partir del segundo trimestre el estudio y implantación de servicios complementarios de mediación en el ámbito social y en el ámbito mercantil que existieron o por lo menos tuvieron experiencias piloto en el pasado

retomarlas en la medida en que las disponibilidades presupuestarias lo hagan posible pero es voluntad de gobierno en el contexto general de la difusión y de la promoción que quiere

trabajar también en el terreno de los servicios de mediación públicos en estos dos ámbitos social y en el mercantil y en la medida insisto de que las disponibilidades presupuestarias lo hagan posible intensificar

habida cuenta de que efectivamente los servicios existentes hasta la fecha arrojan todos casi de manera inequívoca resultados positivos la semana pasada en una comparecencia que llevé a cabo

de instituciones hablaba entre otras cosas de los resultados que está arrojando la mediación en el ámbito de la justicia juvenil unos resultados excelentes porque está

índices de éxito se sitúan entorno al noventa por ciento lo que significa que solamente el diez por ciento de los supuestos de los hechos delictivos cometidos por jóvenes infractores van directamente a la vía judicial el noventa por ciento se resuelven

un resultado excelente positivo que todo el mundo valora y toma en consideración por tanto en fin insistiendo en lo dicho el gobierno

de mediación y yo creo que la cámara tiene posibilidad ahora de estudiar en el contexto de la ley sobre el derecho civil vasco la posibilidad de desarrollar mecanismos propios
de mediación para la resolución de los conflictos que pueda suscitar la aplicación de ese derecho civil muchas gracias eskerrik asko erkoreka jauna

quien cuando fue designado para el puesto de responsabilidad que ocupa en relación con el comercio europeo se autodefinió como el campeón de las multinacionales y dejando también al margen su causa judicial pendiente por fraude fiscal con la hacienda belga que ya daría por sí para entender o por lo menos para interrogar o interpelar en este caso a la consejera sobre cuál era la justificación

con los objetivos nosotros sí que queremos preguntarle una serie de cuestiones al hilo de esta intervención y lo hacemos con una voluntad sabemos que el tema es bastante árido

sino por quienes están ideando este acuerdo se empeñan en que este tema sea demasiado árido como para que los ciudadanos y ciudadanas de la unión europea entiendan poco o nada y así

de muchos ciudadanos y ciudadanas europeas por eso la voluntad de esta interpelación o el objetivo es poder aterrizar poder comprender en lo concreto en qué nos afecta y en qué no nos afecta este acuerdo de asociación trasatlántica para el comercio y la inversión que

y que usted de alguna manera con sus palabras sitúan no solo con la importancia que en esta ocasión ambos le dan sino con esas ventajas que se señalan y quizás lo mejor para poder hacer ese debate sería que nos preguntemos realmente qué es la asociación trasatlántica para el comercio y la inversión para nosotros desde luego no es

en primer lugar porque dicho acuerdo el acuerdo la asociación trasatlántica para el comercio y la inversión es un acuerdo que se está fraguando de espaldas a la ciudadanía

y digo de manera intencionada porque desde el año dos mil doce que es cuando arranca todo el proceso

finalmente en marcha en junio del dos mil trece se han mantenido más de doscientos reuniones más de doscientos seis reuniones citan algunas fuentes

se han mantenido con lobbies el noventa y tres por ciento de las mismas todas a puerta cerrada se va conociendo de ellas en función de las filtraciones y entiendo que del buen hacer

de los participantes o del buen hacer periodístico en cualquier caso creemos que dicha opacidad no puede redundar nunca en beneficio de la ciudadanía tampoco

este proceso de reflexión arranca en junio del dos mil doce y lo arranca porque tanto el partido popular europeo como el partido socialista europeo es decir las dos formaciones políticas que dentro de la unión europea avalan una salida dentro del propio modelo a la crisis económica que el modelo ha generado es decir una salida dentro del capitalismo a la crisis del capitalismo

unión europea y los estados unidos de norte américa esa es la lectura inicial que da pie a todo un proceso

que se fortalece y toma cuerpo oficial u oficialidad en el dos mil trece y que pretenden

decir ya y puesto en marcha es decir en carácter operativo en el dos mil dieciséis para ello o para justificar esa celeridad

lentitud pero que para lo que cuesta mover una realidad como la realidad europea parece que es una celeridad bastante importante señalan la necesidad como justificación real de no perder liderazgo frente a china y los llamados brics es decir los países emergentes

para evitar también la caída del dólar en el peso de la economía global y para que no deje de ser moneda de referencia

y también señalan quizás por aquello de tenderle un lazo o un envoltorio bonito a la unión europea que es para evitar que en el dos mil cincuenta la economía europea no pierda dimensión y peso en el conjunto de las economías mundiales pujantes esa es la lectura por tanto es una lectura claramente geoestratégica es una lectura que se hace desde esa dimensión y que además certifica

nada se dice de generar el área más grande del planeta

lo que importa es la competitividad lo que importa es la competencia con china una contraofensiva geopolítica en toda regla pero como esos argumentos probablemente son áridos

lo que hacen es dar una lectura propagandística a dicha cuestión que aterrice en la preocupación de lo concreto de lo cotidiano esa supuesta necesidad y se nos dice que dicho acuerdo el acuerdo de asociación trasatlántica para el comercio

y que va a sostener tasas de crecimiento para los países de la unión europea por encima del uno por ciento quien dice eso es un gabinete a través de un estudio que ha sido financiado y no nos parece baladí señalarlo por barclay

y por city group es decir grandes entidades bancarias

del atlántico que parece que pueden tener algún interés como luego señalaré en la firma de este acuerdo y sin embargo esas

y el crecimiento anual superior al uno por ciento en el ámbito de la unión europea choca de manera frontal con un estudio de impacto interno de la propia comisión europea que en el dos mil trece señala que el crecimiento estarámás cerca del cero coma uno que del uno por ciento y que en cualquier caso conviene señalar y

productos madereros y papel y empresas de comunicación y servicios señora consejera cree

de la órbita crítica al capitalismo que seguirá redundando en beneficio de las pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas vascas

del conjunto de las pymes de este país cree que ese acuerdo sigue siendo tal y como lo señalaba el cuatro de marzo un buen acuerdo para la ciudadanía de este país

lo que convenga poner encima de la mesa es quiénes impulsan este proceso lo he señalado antes con el número de reuniones y el protagonismo en ellas de los lobbies lobbies que reúnen en asociaciones como el consejo empresarial transatlántico o business europe esos son

de los tiempos y de la política concreta la propia comisión europea lo dice y lo cito textual la barrera comercial más importante no son los aranceles que se pagan en la aduana sino los obstáculos detrás de las fronteras tales como las diferentes normas laborales ambientales y de seguridad

es reducir los costes y retrasos innecesarios para las corporaciones esta es la verdadera lectura y esta es la verdadera causa a la que obedece dicho acuerdo que entiendo en nada redunda en beneficio de la ciudadanía

que quienes concentran ya demasiado poder en sus manos es decir las élites financieras y económicas

cuando lo que vemos es que su práctica de expansión de sus beneficios pasa por delante de los derechos sociales y laborales de la población esa es la foto no nos la inventamos nosotros pues eso es lo que dice dicho acuerdo porque qué supone la práctica la equiparación de la legislación y la liberalización de nuevos sectores que

este acuerdo la pérdida de derechos laborales estados unidos no reconoce muchos de los convenios de la oit de la organización internacional del trabajo la troika exige bajadas salariales y flexibilidad laboral supone también la rebaja de las normas ambientales porque quieren eliminar el principio de precaución el principio de precaución invocado en la unión europea por muchísimas directivas comunitarias aquí aprobadas por la mayoría de la cámara

de la nula restricción del nulo control que estados unidos tiene respecto a sus productos alimentarios donde la proliferación de productos modificados

podría hacer invadirlo qué decir de la hormona del crecimiento por citar algo

quedaría fuera podríamos hablar también del fracking que también pasaría a ser sacrificado la defensa y la preservación del fracking porque así lo exigieran grandes transnacionales que en su lugar de origen pudieran no tener estas dificultades y así

pero este acuerdo será bueno en la medida en que sea posible ponerlo cuanto antes me hablaba usted justo de la parte

incomoda me hablaba usted de que desaparecen derechos laborales de que la normativa ecológica alrededor del medio ambiente puede ser diferente y por qué no vamos a pensar que vamos a llevar la europea también a estados unidos por qué nos ponemos siempre en la peor de las circunstancias por qué creemos

es que no le entiendo usted me pone allí yo le voy a decir otra cosa a mí

los mismos derechos laborales la misma forma de trabajar que por ejemplo un país como suecia un país como alemania pues quizá lo firmaría ahora mismo y por qué eso es malo para euskadi desde luego desde nuestro punto de vista bajo ningún concepto eso puede ser achacado

por otra parte vamos a mirar las inversiones estamos diciendo que somos un país pequeño que nuestras inversiones tienen que verse fortalecidas por otras inversiones que se puedan realizar a través de otros países necesariamente va a ser malo que estados unidos cualquier país que venga a través de estados unidos como ha podido ser

y que ayuda a crecer nuestras empresas pues no es malo no es malo justo lo contrario si observamos algunos de los datos

el cuarenta y seis por ciento del pib mundial y alrededor de un mercado de ochocientos millónes de consumidores estaría establecido alrededor del eje atlántico

sí es importante porque el mercado se abre porque nuestras empresas tienen otras capacidades que hoy no disponen

van a dejar de aparecer otro tipo de barreras y vamos a ser capaces de además de poder vender de poder atraer inversiones y de poder realizar como euskadi inversiones en otros países

intereses a parte de los bancos del centro de investigaciones de política económica creo que hacía referencia usted a ese estudio intereses tendrán ellos pero interés tenemos todos tenemos que buscar cada uno nuestros intereses y hacer

y que se trabajen con ellos por supuesto pero tener intereses no es malo por sí hay que tener los intereses adecuados a nuestra política de país por supuesto pero desde luego tenemos que conseguir trabajar en ese mundo porque ese es el mundo que existe y el que va a existir y que se mueve muy rápido

de aspectos relacionados con todos esos transgénicos de los que usted estaba hablando vamos a cuidarlos muy bien porque precisamente si algo dice el acuerdo es que eso se va a cuidar de forma específica me habla usted de lobbies que están trabajando pero hacer lobby precisamente se puede considerar desde dos puntos de vista

de sus propios intereses sin llegar a ningún tipo de acuerdo público y en este caso hay una serie de intereses privados de empresas por supuesto pero que van a redundar

si esto es una cámara democrática no me dirá que la comisión europea tiene una cámara no democrática donde no se van a poder debatir donde no se van a poder ver todos estos instrumentos

y todo ello va a redundar en la mejora de la competitividad por supuesto porque es necesaria y porque en nuestras empresas estamos observando que es cada vez más necesario ser competitivo

pero con una implicación positiva para esas negociaciones globales en la unión europea no va a ceder ante estados unidos pero por supuesto vamos a tener que trabajar para que el acuerdo sea lo más factible posible y allí estamos representados todos cada uno con sus límites por supuesto pero cada uno con sus límites vamos a trabajar

en relaciones comerciales estados unidos euskadi hay cuatrocientos once empresas de euskadi que exportan a estados unidos que es poco pero importante

con setenta y tres implantaciones en filiales o en delegaciones

y euskadi es la segunda comunidad autónoma exportadora a estados unidos siendo además y lo he dicho en más de una ocasión el tercer destino de las exportaciones vascas por tanto

no justo lo contrario somos la primera comunidad inversora

y es el primer destino de nuestras inversiones en el exterior luego nuestras empresas euskadi está diciendo con datos que el mercado de estados unidos le interesa

ayudar a que ese mercado sea lo mejor posible por qué no trabajamos por que eso se garantice porque todos esos aspectos que usted decía ligados al mundo agrario

por que no trabajamos de forma constructiva y tratamos de lograr acuerdos

nunca nos va a encontrar en la posición contraria nunca lo que vamos a hacer es trabajar para que ese acuerdo sea lo mejor posible nadie duda de la necesidad de la internacionalización en estos momentos de que nuestras empresas estén bien posicionadas que sean competitivas nadie no encuentro a ninguna persona en este momento que no observe que eso es lo que hay que hacer todos estamos preocupados por el empleo la competitividad el desarrollo económico del país esta

a futuro en la que todos tenemos que trabajar y desde luego no me va a encontrar nunca estando en contra ahora sí trabajando porque sea cada vez mejor eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea

sí señora consejera se manifiesta usted muy rotunda en el nunca nos vamos a encontrar usted y yo en posiciones coincidentes y en el nunca

porque desde luego prefiero que no nos encontremos nunca coincidiendo en posiciones a que nos tengamos que encontrar por la necesidad de un mayor drama social

porque su modelo siga funcionando que aceptar de manera critica el modelo estadounidense que es modelo del neoliberalismo salvo que aquí se le quiera poner una txapela general

otra manera pero que en definitiva en resumen y en esencia es eso porque usted nos señala

lo que estamos señalando es que existen experiencias y no vale no mencionarlas

y sin mencionar la consecuencias que ha traído para la parte más débil del tratado que era méjico pregunte en méjico pero no a cualquiera el propio u otro agente qué señalan

pero que incluso ha llevado a niveles de pauperización de los salarios laborales en estados unidos esa es la realidad de esos acuerdos bilaterales o esos acuerdos multinacionales de comercio no nos la estamos inventando nosotros y nada hace indicar que vaya a ser diferente

bueno para nuestra economía nosotros le hemos señalado cuestiones que no nos las hemos inventado eliminar el principio de precaución es un riesgo

lo dirán en el parlamento europeo porque supone que todo lo que ha venido trabajando la unión europea para preservar determinados niveles

tenga que eliminarse y no es un capricho porque usted me señala una negociación abierta y eso me preocupa más es probable que usted conozca datos que si no llegan a existir

yo no lo conozco yo he tenido que recurrir a un montón de fuentes para poder sacar lo que de filtraciones parece que se está negociando ha habido doscientos reuniones ciento noventa y tres con lobbies usted parece que lo conoce póngalo a disposición de la ciudadanía vasca no hagamos ese proceso tramposo de decir que es democrático porque al final llegará cuandoel acuerdo entre estados unidos

una serie de cláusulas innegociables que no pueden desaparecer del acuerdo para que luego sea ratificado

debatámoslo socialmente veamos en qué afecta a todos los sectores que yo he señalado o en qué no afecta y puedo estar haciendo alarmismo

por lo menos en el mecanismo democrático pero no se está haciendo no se está haciendo y se nos señala que esto es necesariamente bueno para la empresa vasca yo insisto aparte del principio de precaución explíqueme en qué es bueno para la empresa vasca que se sea

y así se señala en diferentes informes exige en relación con la propiedad intelectual no estoy hablando solo de lo que tiene que ver con lo que acaeció con snowden

en defensa del medicamento genérico señala en qué es bueno que se impida el acceso a los medicamentos genéricos para la población europea porque esa es una de las exigencias que está poniendo la industria farmacéutica otro lobby de estados unidos en qué es bueno

es bueno que las multinacionales las transnacionales en virtud de un mercado desregulado donde no existen o se puede pasar por encima de las normas propias de los estados para preservar sus líneas de actuación pueda intervenir en todos los servicios públicos en la sanidad en el agua en la energía eso es

yo me temo que no pero hay un elemento muchísimo más preocupante y es que en todas las informaciones a las que hemos podido tener acceso igual usted tiene más y nos lo puede corregir

estado inversor en virtud de la cual se quiere crear un tribunal que pase por encima de las normas de los estados es decir una nueva pérdida de soberanía de los estados

de los mecanismos de defensa de los estados eso sí más o menos democráticos pero elegidos por los ciudadanos y que estén al servicio en este caso de los intereses de las transnacionales

por ejemplo el fracking lo he señalado antes si aquí ustedes o cualquiera determina que el fracking es nocivo para nuestro medioambiente pero ese tribunal en función de una inversión de alguien que es muy importante como texaco determina que tiene la razón

si los bancos que han pagado el informe al que antes he hecho alusión determinan que en principio de la lesión que se les está generando a sus líneas de actuación no pueden

eskerrik asko presidente andrea bueno creo que no tengo que repetir

que nuestro modelo de desarrollo no es ese al que usted hacía referencia siempre hemos trabajado como gobierno este y anteriores por un modelo de desarrollo humano sostenible desarrollo humano y sostenible las tres palabras y creo que hasta podemos estar de acuerdo

la de desarrollo la de personas y la de que sea sostenible evidentemente pero la de desarrollo no nos olvidemos me habla de lo malo que es el nafta del empobrecimiento terrible solamente le voy a decir una cosa méxico crece al seis por ciento ya nos gustaría crecer a la mitad en este momento

y me habla de precaución y de preservar y por supuesto que vamos a estar de acuerdo vamos a tener todas las precauciones pero tenemos que estar trabajando en ese documento para poder establecer esas medidas de precaución y de preservación y lo que se pretende entre otras cosas es regular en materia internacional de comercio de acuerdo con estándares y normativas de calidad

que ya existen es decir no dar un paso atrás sino mantener las que tengamos y tratar de llevarlas al máximo de amplitud por supuesto ese es el objetivo usted me está hablando de un determinado comité evidentemente va a haber intereses privados en este caso muchos como los hay siempre

en esos dos acuerdos de la unión europea acaso no se ha preservado los intereses de la ciudadanía de toda europa acaso en el acuerdo con corea del sur nos estamos saltando por encima las normativas acaso en el acuerdo con méjico nos estamos saltando por encima las normativas no

y siempre en cualquier tramitación en cualquier ley incluso en este parlamento habrá intereses y vendrán personas a analizar

que la ley que salga de este parlamento después salga como a esos determinados intereses

usted lo conoce perfectamente luego en el momento que haya que trabajar esto en la comisión europea queremos estar allí y seguramente su representante en la comisión europea querrá estar allí querrá trabajarlo me costa usted me está hablando de que no conoce

habla mucho para no conocer el documento luego me temo que algo debe conocer nosotros lo único que pretendemos insisto es garantizar el libre comercio sí

fuera o bastante alejado de los centros de decisión del mundo y queremos volver a recuperar posición y esto nos ayuda eso no significa que la calidad la normativa y todo lo que hemos trabajado hasta ahora no esperemos que se mantengan no solo mantenerse sino ser mejoradas y evidentemente cuando hablo de que

sé que nunca es una palabra que no debemos pronunciar evidentemente pero desde luego nuestro modelo económico no va a cambiar va a ser este el del desarrollo humano sostenible

perfecto pero desde luego vamos a trabajar en este acuerdo por supuesto para que sea el mejor posible para nuestro desarrollo y el de nuestras empresas garantizando su continuidad y no solo su continuidad sino su crecimiento porque cuanto mayor sea el mercado mundial no solo mejoraremos nosotros sino que además contribuiremos con nuestras inversiones y nuestro trabajo a mejorar las posiciones de otros países que no olvidemos que a través de este acuerdo lo que se pretende es llegar también a todo

un ámbito muy importante en el que tenemos mucho que hacer mucho que colaborar

ese es nuestro objetivo y ahí si vamos a continuar por supuesto que sí eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamabosgarren puntua galdera

bai egun on señorías el siete de noviembre de dos mil trece se aprobó en esta cámara una proposición no de ley que instaba al gobierno vasco a que en colaboración con las diputaciones forales y ayuntamientos y en función evidentemente de las competencias

un plan especial contra la pobreza y la exclusión social para aquellos municipios y comarcas que por circunstancias especiales precisen de una acción coyuntural a corto medio plazo

viven en riesgo de pobreza en euskadi es decir un siete coma tres por ciento del total de la población vasca que no dispondría de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y hablamos de un setenta y ocho por ciento más que en el dos mil ocho y hoy estamos en dos mil catorce con el añadido también

de pobreza personas que trabajaban que se han quedado sin empleo que han terminado de cobrar la prestación por desempleo familias que viven del subsidio de la renta de garantías de la

que son la alimentación y los gastos propios de la vivienda y ante esta situación entendemos que es imprescindible que el departamento de empleo y políticas sociales asuma

por eso preguntamos al ejecutivo vasco si se ha elaborado el plan

podemos estar de acuerdo con muchas de las cuestiones que usted está trasladando pero lo cierto es que se presentó hace dos días en la comisión de instituciones e interior el informe del grado de cumplimiento de las iniciativas parlamentarias correspondiente a este año dos mil trece

plan especial contra la pobreza y la exclusión social y también las medidas para hacer frente a la pobreza infantil se indica que se está elaborando

que dicen ustedes que se está elaborando me refiero a saber cuándo estará terminado las medidas que incorpora también para hacer frente a la pobreza infantil y cómo lo van a poner en marcha porque independientemente a los efectos de la crisis en nuestra

más sentido y porque la pobreza y la exclusión social son las consecuencias más dramáticas de una crisis que por desgracia está afectando cada día a más

autónoma y es cierto que hasta el momento el sistema de garantía de ingresos parece haber tenido un impacto positivo

llegan a fin de mes con dificultad o mucha dificultad y la crisis ha multiplicado el número de familias vascas sin recursos suficientes para atender a corto plazo sus gastos habituales

y del complemento de vivienda las entidades y las organizaciones sociales advierten del riesgo de cronificación en el sistema de las personas que están en situación de pobreza y exclusión social y en este momento tenemos ochenta y cinco mil parados vascos cobrando una prestación por desempleo

en paro que no cobra ningún tipo de prestación y dependen efectivamente del sistema de renta de garantías y prestación de complemento de vivienda y también de las ayudas de emergencia y aún así no todos llegan a fin de mes por eso ahora cobra sentido que se ponga en marcha ese plan especial contra la pobreza y la exclusión social así que yo solo les pido que pónganlo en marcha

muchas gracias señora presidenta buenos días de nuevo señorías señora consejera

señor consejero

en este parlamento del sin duda museo del mejor artista vasco de todos los tiempos y sin duda uno de los mejores museos que aunque cerrado existe hoy en españa

novena legislatura se tramitaron se debatieron aprobamos distintas iniciativas en relación con la situación de cierre al público del excepcional

también se sustanciaron interesantes comparecencias en la comisión de cultura de esta cámara la comparecencia de la consejera de aquel entonces el tres de

también muy interesante e ilustrativa de los representantes de la familia chillida el veinticinco de mayo del dos mil once también

y se aprobaron diferentes textos que también de referencia es decir el pleno del parlamento vasco de tres de febrero de dos mil once

el parlamento vasco instaba al gobierno vasco a que junto con la diputación foral de gipuzkoa y eventualmente si se acuerda con otras administraciones públicas implicadas acuerde con la fundación eduardo chillida

y participado por las instituciones públicas que permita la reapertura del museo mediante una fórmula que garantice su viabilidad económica y de gestión

de este espacio museístico y además se instaba en aquel entonces y es bueno recordarlo hoy

al gobierno vasco a que si como resultado del acuerdo las instituciones públicas participasen en la gestión y del patrimonio del museo chillida leku este pase a formar parte de la futura red de museos de euskadi

también la comisión de cultura y juventud del diecinueve de octubre de dos mil once aprobó el siguiente texto el parlamento vasco insta al departamento de cultura del gobierno vasco y a la diputación foral de gipuzkoa a retomar cuanto antes las negociaciones con la fundación eduardo chillida pilar belzunce para lograr la más pronta reapertura del

mediante una fórmula de futuro que garantice su viabilidad económica y de gestión además el parlamento ratificándose en la proposición no de ley aprobada el tres de febrero

la unidad permanente de la colección en los actuales terrenos y así mismo a acordar la responsabilidad

seguir transmitiendo con coherencia y dignidad el proyecto original

y puso en marcha son declaraciones de este parlamento de su pleno de su comisión aprobadas

marcaban una posición una posición política en relación con una realidad cultural que lamentablemente no estaba a disposición del público

y que sigue igual el pasado día cuatro de marzo en comparecencia parlamentaria de la consejera

referencia importante por su parte a que el departamento estaba trabajando para empezar a negociar que el museo pase a manos públicas una referencia importante y novedosa de alguna manera o sea que yo creo que en ese sentido hay que buscarla

de la comparecencia en la que nos encontrábamos seguramente pero sí que hemos querido con este planteamiento que el gobierno prepare una respuesta a esa mención que realizó en la comparecencia aquella está claro que el gobierno y la diputación foral de gipuzkoa son

decisiones efectivas y definitivas en relación con la vida con el mantenimiento de esa excepcional infraestructura artística

ante esa aparente decisión del gobierno vasco de enfocar el futuro

entendemos que abordando un necesario y oportuno proceso de negociación

obtener las claves de toda esa cuestión ha habido otras iniciativas parlamentarias también en este

en esta legislatura respuestas a preguntas

se han hecho queda también una respuesta a una solicitud de información del señor maneiro en relación con el informe

adjudicado a la empresa a la consultoría de temas de patrimonio lord cultural resources y bueno en ese sentido pues bueno también estamos a la espera de conocer los extremos o

que realiza el informe sobre estas cuestiones pero volviendo al tema y sobre todo al tema de la interpelación puesto que las declaraciones ahí están

pues sí que tenemos interés y queremos conocer para saber y para

cuáles son los propósitos del gobierno en relación con el proceso de adquisición

y los planteamientos y condiciones en que se encuentra

o su enfoque previo no queremos ser imprudentes ni interrumpir nada pero usted nos dijo cuál era su intención

recibir sus explicaciones muchas gracias eskerrik asko barrio jauna uriarte andrea zurea da hitza

y considero que en este capítulo es unánime el consenso de todos los grupos políticos instituciones y ciudadanía

un legado de extraordinario valor cultural y artístico la última gran obra de un escultor único y de un vasco universal un legado que merece todo nuestro respeto admiración cuidado y esfuerzo ya en mi primera intervención en este parlamento

anuncié cuáles eran mis intenciones con respecto a chillida leku anuncié entonces mis deseos de retomar el diálogo con la familia chillida como primer paso para escuchar en primer lugar pero también para proponer posibles salidas a la situación de impás

de un diálogo fructífero es la confianza mutua y la discreción

la intimidad y la serenidad que un proceso de estas características requiere creo no equivocarme al afirmar que todos somos conscientes de la complejidad de la situación

con un déficit de más de dos millónes de euros en diez años usted conoce bien el enorme esfuerzo que la familia chillida se ha visto abocada a realizar para mantener chillida leku

gracias señora presidenta muchas gracias señora uriarte por

de que estén avanzando y además porque veo que están avanzando porque veo que están actuando

a que sigan avanzando por ese camino del entendimiento y la

en el marco de la discreción en ese contacto complicado efectivamente como usted ha dicho somos conscientes también nosotros de la complejidad de la situación

sí que queremos respetar desde luego ese ámbito de negociación pero queremos impulsarlo y queremos que

que lo estamos haciendo y que nos preocupamos por ese tema y que lo vamos a seguir tratando de controlar respetando ese ámbito desde luego de discreción de prudencia para que el fin sea el mejor o sea que todos los vascos y todo el mundo pueda disfrutar de esa infraestructura excepcional

en las cuestiones de la estricta negociación porque sí que es cierto que

habría muchas preguntas que hacer en relación si es una compra total podrá haber alquileres cómo se asumirá la responsabilidad etcétera no son esas las preguntas que

se deben hacer hoy y seguramente en el marco ese que usted ha pedido de esa discreción y de esa confianza

me gustaría plantearle es decir usted ha dicho que ha habido un documento que ha entregado a la familia etcétera pues ahí está el marco de las negociaciones pero

están actuando conjuntamente están actuando por separado cómo valora usted la implicación

de una institución que también tiene competencias en materia cultural y muchas en relación con esta cuestión puesto que este museo está en el territorio histórico de gipuzkoa

hay buena conexión entre las dos instituciones gobierno vasco

de que esa buena conexión esas sinergias ayudarán además en ese proceso de negociación no cabe ninguna duda porque se asentará mucho más posibilidad de la actuación pública en relación con esa cuestión en ese marco y en esas claves de actuación y de animarles a seguir avanzando decirles que sean ambiciosos que sean abiertos al futuro artístico de este país y a preservar esa cuestión

hay temores el tiempo corre y las amenazas de un museo de esas características cerrado

o haga una apuesta innegable en relación con esa cuestión bien hay riesgos hay temores efectivamente que nosotros también queremos atajar en el marco

hacerle una pregunta porque sí que forma parte del marco de la negociación seguramente pero no de la parte económica o de la parte de la organización cómo ustedes han valorado

con el carácter monográfico del espacio la unidad permanente de la colección de los actuales terrenos y acordar

sobre el legado de eduardo chillida en lo que sea el consejo el comité o la administración que

un posible museo dentro de unas manos públicas es decir ven ustedes bien eso que nosotros y este parlamento ha visto bien porque lo ha aprobado ese carácter esas exigencias

monográfico perfectamente entendible y comprensible además

esa unidad permanente de la colección en los actuales terrenos y esa responsabilidad dentro de lo que sean los órganos de gobierno futuros

de la familia chillida son cuestiones efectivamente que están ahí

y que entendemos que sí son vistas con buenos ojos por parte del gobierno vasco muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

en el valor del museo y en la necesidad de trabajar por la apertura pero como ya le he comentado todo está llevándose

en un ámbito total de discreción y serenidad por lo tanto nos gustaría seguir trabajando así de hecho

para que podamos ir siempre de la mano en todos los aspectos entonces

iremos informando a medida que puntualmente podamos de las cuestiones que me ha planteado que son alguna un poco más concreta en el caso es cierto

y el gobierno vasco en estos momentos nuestro compromiso tal y como le he citado en mi intervención anterior por parte del gobierno fue ponernos

anterior y ver cómo podíamos seguir avanzando entonces en estos momentos muchas de las cuestiones que usted ha planteado son de las que se están hablando por lo tanto no podemos entrar

se informará y se acordará con ellos también de momento como ya he informado en la primera parte estamos estudiando el modelo de museo

y luego cuál puede ser la fórmula económica pero de momento estamos trabajando y no le puedo dar

señora consejera en sopuerta la oferta educativa que se viene desarrollando en dos centros la escuela infantil pública de la baluga para niños de cero a seis años y el centro de iniciativa social concertado

que tiene una oferta completa de primaria secundaria bachilleratos formación profesional iniciación profesional y también educación para adultos

sinergias conjuntas que han respondido de una manera satisfactoria y completa a la demanda educativa del municipio durante todos estos años y que efectivamente

se enfrentan ahora a un conflicto social educativo en el municipio en este caso enarbolado por un

conocer cuál es la disposición del gobierno la determinación del gobierno para superar ese conflicto y para clarificar
la oferta educativa en el municipio de sopuerta en los próximos años nada más y muchas gracias eskerrik asko oyarzabal jauna

legebiltzar presidente andrea para responder a su pregunta a cerca de la valoración que este gobierno hace sobre la situación de los centros educativos

a fecha actual tiene garantizado el derecho a la educación en los términos establecidos en la normativa vigente como usted sabe el derecho a la elección del centro educativo

en este sentido la propia ley dispone que la prestación del servicio público de la educación se realizará a través de los centros públicos y privados concertados

todas las etapas educativas obligatorias educación primaria y educación secundaria obligatoria o para las que existe compromiso de escolarización aulas de tres cuatro y cinco años

es decir la escuela pública de educación infantil la baluga y el centro educativo san viator que dan respuesta a las necesidades educativas existentes a día de hoy en el municipio

nosotros compartimos la valoración que hace y queríamos escucharlo

como usted conoce la escuela infantil pública de la baluga se edificó en una parcela propiedad del obispado que la cedió gratuitamente

y no ningún otro ciclo porque se trataba de garantizar la continuidad del centro san viator propiedad también de la diócesis en una oferta educativa que está

y por la población de ese municipio de sopuerta las instituciones facilitan además transporte comedor a aquellos alumnos que se quieran trasladar hasta allá a estudiar en una escuela pública son muy pocos apenas

con los dedos de una mano pero bueno es verdad que hace poco más de un año se constituyó una

que recogió mil treinta y tres firmas de un censo

habitantes con ese censo y con una respuesta social de estas características en defensa

centro san viator esa es la demanda de la población y nosotros efectivamente queríamos que usted

seguridad a las familias de que ese va a ser el compromiso del departamento y del gobierno respetar la continuidad de esa oferta educativa respetar también la continuidad de ese proyecto educativo que representa el colegio san viator

años de historia setecientos cincuenta alumnos ochenta trabajadores que es un centro de referencia en la comarca de encartaciones para todo el tejido socio económico

que se ha roto el equilibrio que hay un conflicto social que está enrareciendo el clima educativo entre las familias el propio ayuntamiento denegó en septiembre el uso del patio cubierto de la escuela pública a los alumnos del colegio san viator que lo venían utilizando

es un hecho es un hecho que usted conoce que efectivamente ese conflicto está llevando un enfrentamiento de las familias y de las propias asociaciones de padres nosotros creemos que el departamento debería implicarse de una manera mucho más efectiva

a la comunidad escolar de que esa oferta educativa actual está garantizada y que no va a haber otro tipo de experimentos

benetan dagoen plazen premia ezagutzeko asmoz pero esto no quiere decir que no dejemos de tener nuestra responsabilidad frente a todo lo que

exige y entonces y del seguimiento qué vamos a hacer porque es lo que nos corresponde hacer como gobierno si se concluyera que hubiera una demanda

más allá de lo ya existente en estos momentos somos plenamente conscientes de que resulta condición indispensable la liberación de las instalaciones que nos están demandando por otro lado de las actuales cargar y condiciones derivadas de la escritura

ambas circunstancias el departamento de educación política lingüística y cultura se muestra

para poder ampliar la oferta educativa pública del municipio de sopuerta también en educación primaria

es dar respuesta a la demanda existente cuando esté justificada y eso es lo que nos corresponde como administración pública eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako

el problema reside en que la escritura notarial de donación de los terrenos

y cito textualmente que el terreno donado se destine a la construcción de un centro de enseñanza del nivel de educación infantil así mismo se establece que el incumplimiento por parte del ayuntamiento de cualquiera de las obligaciones faculta a la iglesia católica

para que pueda revocar esta donación y recuperar la propiedad de la finca donada junto con todo lo que sobre ella se hubiera edificado plantado o sembrado

eta lehen esan dudan bezala lo he manifestado claramente cuál es la postura del gobierno vasco

este departamento va a seguir de cerca la evolución de los datos de natalidad

ume ikusiko dugu hurrengo urteetan zer den así como las tasas de escolarización del municipio para ver cuál es la necesidad de las plazas de escolarización por el momento han sido siete

en todo caso si el ayuntamiento lo considera oportuno podrá iniciar los trámites y conversaciones necesarias para conseguir modificar las escrituras si es el caso y si no ponerse de acuerdo con la diócesis

para cambiar el destino del propio edificio requisito indispensable para poder dar al centro educativo la baluga un destino acorde a las pretensiones municipales no es otra en estos momentos

y la diócesis y después en función de cuál sería las necesidades de educación

sí muchas gracias señora consejera espero que no haya ningún grupo parlamentario que me interrumpa con sus exabruptos y en el caso de que se produzcan la presidenta les llame al orden el pasado día tres de marzo señora consejera con la excusa de la celebración en bilbao del

decenas de jóvenes violentos protagonizaron actos vandálicos en la gran vía y el casco viejo

el resultado fue más de medio centenar de establecimientos destrozados desde sucursales bancarias hasta comercios pasando por distintos establecimientos hosteleros los energúmenos llevaron el terror y la desesperación a decenas de ciudadanos

comerciantes clientes y paseantes isiltasuna mesedez los salvajes quemaron contenedores de basura y arrancaron

para hacer añicos cristaleras y puertas de distintos establecimientos pocos locales quedaron a salvo de la violencia de los vándalos señora consejera según datos del ayuntamiento de bilbao estaríamos hablando de pérdidas superiores a los cien mil euros en mobiliario urbano

diecinueve comercios y bares la cafetería del hotel villa de bilbao arrasada literalmente destrozadas puertas del palacio euskalduna

asaltados un vehículo de correos destrozado

diecisiete de ellos quemados seis marquesinas papeleras decenas de parterres etcétera lo que llama la atención

además de estos hechos además de las imágenes además de las fotografías además de los videos es la impunidad con la que actuaron

la impunidad tenemos videos que nos han sido enviados

los videos que han sido trasladados a diferentes grupos parlamentarios las imágenes de televisión los videos lo que ha salido en prensa llama la atención la extraordinaria impunidad con la que esta gente actuó y la pasividad

esto es lo que básicamente llama la atención pasividad

de un mandato del departamento de seguridad un mandato parano actuar una decisión política consistente en no actuar

de modo inmediato el ayuntamiento de bilbao calificó el estallido de violencia como el golpe más duro y violento que ha sufrido el comercio de bilbao

la consejera del departamento de seguridad es decir usted debe explicar

gravísimos acaecidos usted debe explicar la actuación de su departamento y explicar las decisiones políticas que se tomaron los distintos sindicatos de la policía vasca criticaron con dureza el dispositivo puesto en marcha y la estrategia que usted diseñó

criticó el dispositivo policial y pidió el cese del director de la ertzaintza euspel señaló que el departamento de seguridad

dé una imagen paupérrima sorprendentemente sobretodo

y la indignación de los ciudadanos y la propia indignación de los propios agentes

sorprendentemente digo que el portavoz del gobierno vasco señalaba al día siguiente de los hechos que el dispositivo funcionó el dispositivo

que funcionó ya que según dijo evitó que la algarada se extendiera a toda la ciudad y la ciudad acabara en llamas estas son las palabras

todo el mundo pudo ver que el dispositivo no funcionó los sindicatos han dicho que el dispositivo no funcionó o que al menos el dispositivo tenía que haber sido otro

habidos no se le ocurre decir otra cosa que sí que fue un éxito desde entonces los acontecimientos se han sucedido y se han conocido nuevos datos y hechos que exigen que la consejera de seguridad responda urgentemente a la sociedad y explique

en bilbao más allá señora consejera de las explicaciones que pudiera dar en la comparecencia del día treinta y uno en la comisión correspondiente si es que para entonces usted sigue siendo

cosa que ciertamente dudo dado los hechos y dado como tiene organizado el departamento y los líos internos que tiene usted dudo que pueda usted seguir siendo consejera en las próximas semanas pero en todo caso

por eso le interpelamos para que explique la actuación de la ertzaintza en ese día para que explique

los errores cometidos los pactos alcanzados señora consejera qué pactos alcanzó con quién cómo para qué las ordenes

la verdad de los hechos ocurridos nada más y le escuchamos atentamente si es que algunos parlamentarios nos lo permiten gracias eskerrik asko maneiro jauna

legebiltzarkideok egun on señor maneiro le recuerdo algo que ya he dicho públicamente en más de una ocasión las medidas de seguridad que se articularon

entre los días dos y cuatro de marzo en bilbao fueron excepcionales y fueron adecuados a lo que

requiere las medidas de seguridad se coordinaron se diseñaron y se ejecutaron operativamente con la vista puesta en tres objetivos por una parte establecer operativos de seguridad y de protección

la experiencia de otros eventos similares que han sucedido en otros lugares del planeta ya dejaba entrever que esto no era una tarea fácil que iba a tener su

también en bilbao el segundo objetivo importante garantizar la seguridad ciudadana también en aquellas zonas pero al mismo tiempo ajenas a la celebración del foro con el objetivo de que la vida cotidiana habitual de la ciudad no tuviera que soportar de lo imprescindible los lógicos efectos colaterales de un evento de estas características y en tercer lugar otro objetivo asimismo importante es preservar los espacios de seguridad necesarios para el desarrollo de las manifestaciones de protesta manifestaciones de protesta comunicadas preceptivamente convocadas y promocionadas con mucha antelación y que buscaban como usted sabe ejercer la legítima protesta política

o sindical con motivo de la reunión de mandatarios y personas relevantes del mundo de la economía esos días como decía del dos y tres de marzo en bilbao con ocasión del global forum

con todos los matices y todas las concreciones que la organización de los operativos de seguridad requerían para lograrlos en la mayor medida posible

no era fácil y sinceramente creo que a estas alturas tampoco usted tiene motivos para dudar de que el logro fue más que aceptable

e insisto sin restar ni un ápice de importancia a los graves incidentes que se vivieron en momentos puntuales y en zonas puntuales y concretas de la ciudad

evidentemente algunos de los hechos que se produjeron el tres de marzo en bilbao

graves por sus efectos económicos principalmente en comercios usted lo ha dicho entidades bancarias

pero graves también desde el punto de vista de los riesgos de seguridad y protección ciudadana incluidos los riesgos que tuvieron que afrontar los y las agentes de la ertzaintza con el resultado bien conocido

y horas de tensión emocional y esfuerzo físico eso es evidente y por su gravedad los acontecimientos motivaron lo que ha motivado

la reflexión pública el debate de sobre cómo actuar en estas situaciones como las que se produjo en la gran vía de bilbao cómo se debe actuar en estas ocasiones esta misma interpelación parlamentaria que usted me hace hoy las solicitudes de comparecencia en comisión y cómo no podía ser de otra manera también

de lo ocurrido nos hacen ir hacia esa reflexión desde ese primer momento se investiga y se analiza lo sucedido

sobre todo para tratar de identificar y de detener a quienes generaron aquellos inconcebibles e incivilizados

generando además situaciones de peligro e inseguridad ciudadana usted ya lo sabe y así lo ha dicho señor maneiro que el día treinta y uno de marzo compareceré a petición propia ante la comisión de seguridad y justicia comisión

grupos políticos han solicitado mi comparecencia y es allí en la comparecencia del día treinta y uno de marzo a la que me remito allí podré explicarle con más profundidad los resultados del análisis y de la

sobre lo ocurrido y en segundo lugar la investigación para detener e inculpar a las personas que participaron en aquellos actos vandálicos y también y este es un objetivo tan importante para el departamento como para la propia ertzaintza sobre todo para disipar

han querido generar sobre esa actuación sospechas de las que en alguna medida o en gran medida usted se ha hecho eco hoy aquí y entiendo que de una manera bastante irresponsable eskerrik asko

gracias presidenta señora consejera le faltaban cuatro minutos y medio para poder seguir explicando la situación y no ha querido hacerlo y pospone sus explicaciones en una comparecencia posterior creo que es una falta de respeto

a un parlamentario que le realiza una interpelación en este pleno de control ya habrá después otras comparecencias dice que se tenían tres objetivos buen

legítimas y finalmente garantizar la seguridad ciudadana usted cree que se garantizó la seguridad ciudadana en la gran vía y en el casco viejo usted cree que se logró ese objetivo se garantizó la seguridad de los ciudadanos de verdad piensa usted eso

en absoluto y dice que la tarea no era fácil ya pero es que es su tarea organizar bien el asunto si no están capacitados retírense y váyanse a su casa

pero se tenía que haber hecho bien tenía que haber una voluntad política de hacer las cosas de manera organizada bien y ustedes no lo han hecho no lo han hecho porque no lo han querido hacerlo ante la desesperación de los agentes

ante la desesperación y la indignación de los ertzainas que están protestando y han protestado estos días pasados ante la incompetencia supina del departamento de seguridad que estamos padeciendo esta es la realidad usted habla de momentos puntuales de hechos puntuales no fueron momentos puntuales ni fueron hechos puntuales fueron hechos terribles que la ertzaintza tenía que haberlos impedido y no lo hizo por qué

no escoltó esa manifestación señora consejera

no escoltará esa manifestación ya le digo partidos políticos

denunciaron la inacción policial evidente que todos los ciudadanos pudimos ver especialmente los agentes

absolutamente indignados tenemos varios precedentes de su incompetencia supina el partido euskadi bolivia en el que el departamento que usted dirige pactó con una plataforma el dispositivo de seguridad a medida del colectivo abertzale esai que se saldó

y tenemos otro acontecimiento reciente como fue la detención en bermeo de urtza alkorta en la que

una liturgia para su detención que lejos de fortalecer el estado de derecho

proclama nada menos que a la portavoz de eh bildu como mediadora

y la dirección del departamento de seguridad y ahora estos hechos de bilbao nos parece absolutamente inaceptable señora consejera pactaron desde el departamento de seguridad con la plataforma gune la no intervención

tiene usted previsto depurar algún tipo de responsabilidad

vea la conversación a la que hemos tenido acceso entre un responsable de una de las unidades que estaban en la calle y un compañero se ordenó por jo acudir a dos y mesa de crisis anuló orden

nuestro tenían localizados a los alborotadores así se dijo por emisora

no autorizó intervención para detenerlos señora consejera tendrá que explicar esto

y otras imágenes que tenemos una orden clara por lo tanto de no actuar y esa orden está dada por la mesa de crisis pese a que los agentes de paisano

los violentos ahí están los hechos ahí están las imágenes se pretende huir del delito se pretende satisfacer a algunos

incompetencia absoluta señora consejera no son ustedes profesionales a la hora de planificar la seguridad que demanda una sociedad moderna

intereses políticos priman pactos políticos

usted señora consejera debe dimitir porque está incapacitada para seguir siendo consejera del departamento de seguridad en año y medio en fin tres escándalos evidentes y el último los sucesos de bilbao un pacto entre usted

para no actuar y para abandonar a ciudadanos a su suerte incompetencia supina usted señora consejera debe dimitir eskerrik asko

presidente andrea habla usted de inoperancia permisividad inacción de supuestas órdenes permisivas hacia la violencia y sin más conocimiento de causa que las hojas de propaganda

sin más información que la basada en la técnica del trazo grueso del bulo por el bulo y esto

más contundente más agresiva ante la violencia menos permisiva frente a determinadas formas de pensar y de actuar pero este no es el camino señor

de renovación reorganización y adecuación a las necesidades de seguridad que día a día nos demanda la sociedad vasca y ese camino tiene sus dificultades la tuvo en bilbao el día tres de marzo

afrontar y superar el reto le voy a reiterar lo que ya le he dicho antes la labor operativa de la ertzaintza de cara al global forum spain de los días dos tres

garantizar la seguridad y desarrollo del propio foro tanto la seguridad de las personas que participaron en él como la seguridad y cumplimiento del programa de los actos previstos esos dos objetivos se alcanzaron con eficacia operativa segundo objetivo que la inmensa mayoría de bilbaínos y bilbaínas ajenos al ajetreo

pudieran desarrollar sus actividades cotidianas con normalidad pero sí es verdad

fueron más que considerables y en tercer lugar nos correspondía velar por el normal transcurso de las manifestaciones de protesta previamente comunicadas y programadas

de una de estas manifestaciones irrumpió un grupo amplío de agitadores violentos

paralizara esa manifestación a la vista del cariz que iban tomando las cosas pero a pesar de las

en cualquier caso ya se lo he dicho antes estamos analizando al detalle las dudas

y sobre todo insisto se mantiene abierta la investigación policial de la actuación de los violentos

requiere de su tiempo se trabaja y se sigue trabajando y el día treinta y uno de este mes aunque parezca un aviso espero poder profundizar en este debate que usted quiere suscitar en torno a la actuación de la ertzaintza en el operativo de seguridad con motivo del global forum spain espero que al menos acuda ese día con menos prejuicios

gracias presidenta señorías señora consejera el ascensor de begoña de bilbao funciona desde mediados de los años cuarenta enlazando la calle esperanza con las inmediaciones del campo de futbol de mallona

es muestra singular del llamado movimiento moderno en dos mil doce transportó casi

de transportes de bizkaia es por tanto una infraestructura de gran importancia para los vecinos de begoña y otros barrios cercanos

presenta una problemática importante necesita obras de rehabilitación y a eso se le suma el anuncio del concesionario el pasado mes de agosto

y que presentó una solicitud de caducidad de la concesión porque alegaba un ahogamiento financiero por varios motivos nuestro grupo el grupo popular considera que es necesario garantizar este importante servicio para los vecinos de bilbao porque es además un reclamo turístico un icono

tomar las decisiones oportunas para solucionar la problemática surgida en noviembre del pasado año en una proposición no de ley presentada en este parlamento nuestro grupo a un acuerdo con el grupo nacionalista y firmamos una enmienda en la que instábamos al gobierno a que en el caso de que el

del servicio decida hacer efectiva su intención de renunciar a la concesión se garantice el servicio del ascensor de begoña en condiciones óptimas de uso

hemos tenido conocimiento de que se ha inadmitido por parte del gobierno vasco la solicitud

por no concurrir las razones esgrimidas por el concesionario y la empresa

ha sido autorizada a incrementar el precio de los billetes pero señora consejera la problemática no se ha despejado la incertidumbre persiste

son muchas las dudas muchas las preocupaciones que tienen los vecinos de bilbao sobre el mantenimiento de este importante medio de transporte

ha manifestado también su preocupación repetidas veces por la permanencia de este servicio en buenas condiciones

le formulo la siguiente pregunta es criterio del gobierno garantizar el servicio del ascensor de begoña en condiciones óptimas de uso en el caso de que el concesionario del servicio decida hacer efectiva
su intención de renuncias a la concesión muchas gracias eskerrik asko

como usted bien sabe y como bien nos ha explicado la concesión de la explotación

del ascensor data de mil novecientos cuarenta y siete es una concesión que se otorgó para noventa y nueve años por lo tanto

dos mil cuarenta y seis ese es el año en el que finalizará la concesión la solicitud de caducidad fue presentada por el concesionario fue informada

bien conoce compartimos con usted la preocupación tanto por el mantenimiento de la infraestructura como por la explotación de ese servicio y para dar el servicio correcto a los ciudadanos

estamos al habla con el concesionario estamos trabajando con él para establecer para ver cuáles son los términos de la continuación de ese servicio el

esa solicitud de caducidad de la concesión pero ha sido informada negativamente como decía por nuestros servicios jurídicos

que se podrían abrir a partir de ahí puede ocurrir que el concesionario proceda al cierre unilateral del servicio

al cual está obligado por esa concesión administrativa de la que es titular estaría incurriendo en un incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales pondríamos en marcha los procedimientos legales correspondientes si esto ocurriera

el gobierno garantizará la respuesta adecuada a las necesidades de movilidad de las personas actualmente usuarias del ascensor de begoña y todas aquellas personas que necesitan comunicarse

población son personas con discapacidad intelectual que entre otras cosas precisan de un sistema estructurado de apoyos para conseguir su autonomía individual incluida

para el máximo desarrollo de su proyecto vital individual para esto es preciso garantizar el acceso a la enseñanza inclusiva de calidad y gratuita

y protegido como en el sector público y un sistema de acceso a la vivienda que recoja todas las circunstancias

envejecimiento activo es desde

en un esfuerzo por visibilizar por un lado la realidad de este colectivo

de la voluntad de las personas con síndrome de down que trabajan día a día para conseguir el sitio

en la sociedad y por otro lado junto a ellas la de aquellas personas que trabajan a favor de su autonomía y empoderamiento personal contribuyendo a aumentar la conciencia pública